a la orden del día resoluciones judiciales a la carta eta gero eta gehiago adibide hauek

gustatzen el estado puede anular puede suprimir puede revocar puede suspender

lo que esta cámara decide lo que el gobierno vasco quiere hacer y no pasa nada ez da ezer gertatzen eta zer da

behar dituen guztiak ere bertan behera geratzen direla las decisiones que toma este parlamento con las diferencias que cada uno tiene normalmente se toman pensando en que los ciudadanos y las ciudadanas de este país de la comunidad autónoma vivan mejor y en el ejercicio de nuestras competencias y nuestras soberanía

los derechos básicos ataca nuestras instituciones y estamos siempre a expensas de que al estado español le guste más o menos lo que hacemos

eta hori esateko eta argi ikusteko kontuan hartu behar dena da gauza bat el gobierno de españa el gobierno del reino de españa

setenta efectivamente han reconocido de derecho pero no de hecho las competencias de esta comunidad autónoma

permiten afirmar que muchas de las actuaciones se han llevado a cabo para intentar eliminar esas competencias y

que en ciertos temas en los que a ellos creen que les afecta directamente la soberanía es de ellos y nos lo dicen todos los días

pero pese a la permanente afirmación de que hay que cumplir las leyes

de forma contumaz por el estado una desobediencia a una de las leyes políticas básicas de la estructura del estado a una de las básicas en segundo lugar tienen otra actuación el gobierno del estado español y el partido que lo sustenta a rebajar y a eliminar las actuaciones y las decisiones de este parlamento y lo hace impidiendo el desarrollo normal de esas decisiones y lo hace sometiendo esas decisiones a un tribunal constitucional que constantemente las rebaja y en tercer lugar se dedica

que invaden las competencias de la comunidad autónoma vasca y con ello obliga al gobierno vasco y a las instituciones de la comunidad autónoma a meter un montón de procedimientos reclamando esas competencias esto son decisiones políticas esto no son

y son decisiones políticas que llevan a un incumplimiento de la ley y llevan a un incumplimiento de la ley en también su obligado desarrollo

y han sido acompañadas además de otra actuación desde mi punto de vista totalmente incompatible con el estado de derecho que dice el estado español que es

de las decisiones del estado lo que debiera de ser una actuación

y en interpretación y con respeto de la ley se deriva en una serie de constantes decisiones de ese tribunal orientadas únicamente a ratificar lo que el gobierno del estado español les dice y para ello

de designación de ese tribunal y de la atribución de una serie de competencias que superan a ese tribunal y a los tribunales de esas características y esto supone

del estado democrático que dice españa que es una quiebra en la separación de poderes una quiebra de la democracia y la lectura de esa quiebra

de las consecuencias que tiene esto es la destrucción de la división de poderes en la práctica el tribunal constitucional se ha convertido en un tribunal que actúa a los intereses del gobierno y la segunda es la eliminación de cualquier cauce que posibilite

eta hor nahiz eta toki desberdinetakoak egon siempre ha habido una cosa importantísima que han tenido claro todas las personas y todos los magistrados que han ido allí y si no no tenemos que mirar nada más que lo que ha pasado en cataluña con las resoluciones

era básica porque la unanimidad defiende la posición del estado defiende la soberanía del estado y ataca todo lo demás entonces quién esté cómo esté designado o la representación que haya pues puede no tener

que se ha cansado de hacer votos particulares en ese tribunal y que no ha conseguido en la mayoría de los casos

personas que han estado en ese tribunal que han tenido la misma consecuencia que

en aras al consenso y en aras a buscar una solución y en aras a la buena voluntad que podemos pensar que alguien tiene de que las cosas se cambien y mientras

a otro sí que aceptamos el punto quinto y lo hemos introducido en la enmienda que hemos acordado euskal herria bilduk

euskal herria bildu tampoco renuncia a nada va de aquí a otro sitio que es donde entiende

la verdad es que nos alegra bastante que

tan importante como es la defensa del autogobierno vasco de nuestro autogobierno

con sus matices porque en elkarrekin podemos creemos en él y estamos dispuestos como me parece que hemos demostrado desde que llegamos a esta cámara a mejorarlo

que sirva para mejorar la vida de la gente que la ciudadanía vasca con su participación y con sus aportaciones

pone en duda el orgullo que sentimos las ciudadanas vascas por nuestra soberanía

como dice la enmienda de transacción que hemos acordado este parlamento reivindica la defensa del autogobierno como el derecho la capacidad

y manifiesta la ciudadanía vasca para que las decisiones que afecten a su vida no se tomen nunca prescindiendo de su voluntad y como la garantía de la protección del bienestar y del progreso de la ciudadanía a la que representa es decir ejerciendo la capacidad de decidir

tal y como ya se hace en este parlamento y en el resto de las instituciones vascas gaur legebiltzar honetako gehiengo zabal zabal

decía que hoy nos ponemos de acuerdo claro la gran mayoría de esta cámara porque es obvio que al partido popular ni está ni se espera que esté

responsable como es de los recursos interpuestos de muchos de los recursos interpuestos en contra de nuestras leyes y por ende del autogobierno por tanto de la soberanía de esta cámara que representa la voluntad popular de vascos y vascas algo que

a elkarrekin podemos no le sorprende puesto que el partido popular en esto no se ha movido ni un ápice desde hace muchos años su concepción

del estado es equiparable a su histórico rechazo por una articulación política de la plurinacionalidad incapaces de salirse de una noción de estado

y miope con mayor o menor intensidad en función de la coyuntura y de sus intereses electorales

recurriendo al tribunal constitucional de forma recurrente un tribunal constitucional que no ha ejercido estos años el papel de árbitro que le otorga la constitución

al servicio de los intereses del partido popular no voy a explicar aquí como se conforma ni a descubrir nada nuevo si hablo de un sistema de nombramientos especialmente parcial extremadamente parcial y politizado un sistema

otros partidos de los que hoy se encuentran aquí la incapacidad manifiesta de terminar con la politización de la justicia y con la judicialización de la política es buena muestra del fracaso de la consolidación

basada en la separación real de poderes ez da sorpresa bat guretzat gaur egun

esto a lo que ahora le llaman la tensión recentralizadora quizás debiera ser una pregunta que otros partidos de esta cámara deberían hacerse me refiero a quienes pactan presupuestos

ahora y en el pasado con este mismo partido popular pero que se llevan las manos a la cabeza y aparecen compungidos indignados a día de hoy no creo que en esto al menos en esto

en el pasado pero a algunos no les ha preocupado pactar con este pp ni antes ni ahora es el mismo partido y son las mismas ideas

con las mismas ideas o incluso peor

del pp parece que vienen pisando fuerte y se les están subiendo a las barbas

no vaya a ser que además de por los casos aislados de corrupción

a ustedes por no defender la unidad de españa lo suficiente así que nos podemos encontrar con una dosis extra de recentralización y de hecho ya venimos oyendo

allá por el congreso que ya está bien de catalán que ya está bien de euskera que ya está bien de concierto económico autogobierno y cosas que no son nada liberales y nada de bien

no haber querido un gobierno con esos compañeros de viaje menudos compañeros que nos querían buscar y que por cierto han sido también acompañantes del apoyo presupuestario en madrid nuestro proyecto político

hablamos hoy aquí del autogobierno de todas sin distinción de todas las personas que viven en euskadi un autogobierno que no vamos a aceptar que se ponga en cuestión un autogobierno ni mucho menos que sirva para hacer de electoralismo

ulertzen ez duten eta ulertu nahi ez duten zerbaitekin apostamos por la vía del diálogo para solucionar los conflictos de competencias

el blindaje de las mismas mediante la reforma del actual estatuto mediante mecanismos que aseguren la bilateralidad en base a un respeto mutuo podremos tener muchas diferencias sobre el modelo de país que queremos sobre las políticas a desarrollar

nuestro compromiso para defender los derechos de la ciudadanía vasca un compromiso que llevaremos

sirva por encima del resultado de la votación para constatar la validez del gran acuerdo alcanzado por la ciudadanía vasca hace treinta y nueve años y la reivindicación de sus instituciones

el intento de desprestigio de lo que aquí se hacía el intento de derribar lo que se iba construyendo

físicamente a quienes ocupaban estos escaños por el hecho de hacerlo a nosotros nos parece que este debate es una gran oportunidad para reivindicar la capacidad de decidir sobre muchas cosas especialmente sobre el modelo social que los vascos y vascas hemos querido

desde lo público el derecho a la salud de construir una escuela pública que garantiza el derecho a la educación de hacer posible una policía propia que garantiza nuestra seguridad

único en nuestro entorno que garantiza unos ingresos mínimos de buscar las fórmulas que hoy hacen posible garantizar el acceso a la vivienda de impulsar las políticas públicas

todo esto es lo que ha venido haciendo este parlamento todo esto y más gracias a este estatuto y a una vocación de quienes hemos participado siempre en las instituciones para construir un país en el que quepamos todos y todas

nos ha proporcionado la mayor etapa de progreso y bienestar que jamás se haya conocido en euskadi pero un modelo

ha tenido fallos ha tenido limitaciones y ha sufrido intentos de ser anulado o restringido por quien no es capaz de gestionar una españa plural y descentralizada porque esto es de lo que hablamos hoy y esto no nos pasa solo en euskadi

es algo que por desgracia padecen también el resto de las comunidades lo primero que hay que decir para que quede claro es que el recurso al tribunal constitucional es legítimo

la vía adecuada es la previsión realizada por la propia constitución y asumida por este propio estatuto para poder dirimir diferencias de interpretación

como apunta el grupo proponente a impulso del gobierno central

cuando apreciaba invasión de las competencias propias pero este mecanismo es fallido es lo previsto por la constitución pero la practica está demostrando que no es un modelo garantista ni en la forma en la que se distribuyen las competencias

las diferencias de interpretación así lo venimos señalando los socialistas desde que hace cinco años

definiéramos los aciertos y los fallos de nuestro sistema territorial y concluyéramos que lo conveniente

que zanje precisamente entre otros el problema que ahora estamos discutiendo aquí lo que décimos lo que decíamos y seguimos diciendo es que sería mucho más conveniente en un estado con una vocación de descentralización tan acentuada como es el nuestro

no las competencias exclusivas como lo hace actualmente que mezcla cuestiones de legislación con las de ejecución o las delegables sino un listado preciso y corto de competencias indelegables en manos del gobierno de españa y el resto todas aquellas que las comunidades puedan asumir

clarificación de competencias por tanto acompañadas de garantías de igualdad de derechos y solidaridad entre territorios y con la garantía añadida de mecanismos de lealtad federal mecanismos que resuelvan los conflictos de relaciones que surgen de forma natural entre instituciones y que siempre va a seguir habiendo haber carecido

es lo que ha obligado a acudir de forma recurrente y abusiva muchas veces al tribunal constitucional que haya diferencias debe ser asumido

al tribunal constitucional a hacer una especie de relectura de la constitución sin atender a la voluntad de autoorganizarse de los distintos parlamentos autonómicos es algo bastante más peligroso y lo que no entendemos es la cerrazón de tantos en haber retrasado y ahora en ralentizar la revisión de nuestro sistema territorial

ese incremento de la litigiosidad y si convenimos en que es un impedimento para la proyección de nuestras políticas públicas los socialistas no entendemos que todavía hoy se pongan tantos palos a las ruedas del proyecto compartido y descentralizado que es españa

que insisto en que la tiene el gobierno de españa y los autonómicos y otra muy distinta utilizar este órgano para intentar laminar

hace cuatro décadas que es lo que está haciendo a nuestro entender el partido popular

por desgracia por la inmensa incapacidad que tiene de entender el país que rige un país plural muy plural que pretende dirigir con una única visión la particular la de un partido que por cierto ni estuvo en la gestación del modelo ni en su desarrollo

si ellos tienen el poder en ellas es una visión paralizante y restrictiva en derechos sociales y en desarrollo territorial es la que mantiene cautivo y pone en peligro el proyecto de españa no saber entender cataluña

no saber entender euskadi y lo que aquí nos ha costado construir consensos

es el mejor alimento que han encontrado los partidos que siempre han defendido las tesis de independentistas porque no es entendible lo que hacen por citar un ejemplo reciente

en este caso el de la organización laboral de los empleados públicos de euskadi y que a la vez sin solución de continuidad proponga esas jornadas de treinta y cinco horas que cuestiona

no es entendible que su propia formación en euskadi comparta un proyecto de medidas ambientales adicionales que impidan el fracking y que por otro lado

no es entendible que intente poner coto a dar una solución a las personas que no pueden pagarse un techo bajo el que vivir ni fue entendible aquel empeño en impedir una respuesta rápida

que decenas de miles de jubilados tuvieran que pagar por las medicinas recetadas por sus médicos porque fue aquel ejecutivo el que a lo largo del dos mil doce tuvo que empezar a sufrir la involución recentralizadora

jamás supo utilizar para nada que no fuera laminar derechos

es que aquí estamos decididos a exprimir todas las posibilidades que nos ofrece nuestro estatuto para no desatender

aunque fuera con un esfuerzo mayor y más tarde de lo previsto hoy en euskadi

que no tienen que pensar en dejar de medicarse por falta de recursos

que se buscarán fórmulas de un nuevo de acuerdo con los representantes de los trabajadores para mantener también las decisiones laborales pactadas en el sector público ya ni sabemos siquiera qué idea tiene el pp sobre el país más allá de la cadena perpetua revisable

son ante todo pactos de convivencia pensados para el progreso en sociedades plurales como la nuestra y gestionar la pluralidad es algo que este gobierno desconoce con pocos visos además en el corto plazo de que vayan a corregir esa actitud entendemos muy dañina para todos un gobierno especializado en decir es verdad que con contundencia

lo que no pueden hacer otros gobiernos pero incapaz de plantear una sola alternativa ante todos aquellos que con muchas razones no confían en el partido popular

que nos ofrece el estatuto la mejor herramienta que hemos tenido para la mayor época de progreso y cohesión social para extender derechos y bienestar de la ciudadanía y sirve también para insistir en la necesidad de actualizar esa herramienta y la constitucional con esa misma vocación reconociendo las diferentes sensibilidades e integrándolas en un proyecto

y garantice la igualdad y la solidaridad y los socialistas detectamos que hay una amplia voluntad en esta cámara para emprender un camino renovador

y aprovechamos para volver a invitar a quienes comparten con nosotros que acudir al constitucional para que reinterprete permanentemente nuestras posiciones no es la solución adecuada a que se sumen a las reflexiones abiertas en el congreso para revisar nuestro sistema a que hagan sus aportaciones y a que formen parte de los acuerdos

en gobiernos de coalición en solitario o desde la oposición irá de la mano del resto de la representación de euskadi para defender nuestro modelo singular y la vocación de la ciudadanía de seguir compartiendo un proyecto de progreso

que busca por encima de todo asegurar a todos y todas la sanidad la educación la protección social la vivienda la igualdad de género o un medio ambiente sano

y ofreciendo oportunidades eso es lo que nos ha servido para encontrar un lugar común que es la enmienda de transacción que hoy presentamos

casi cuarenta años después de su aprobación denunciado en multitud de ocasiones por esta cámara

hilabete eskas se le suma en los últimos años una actitud manifiestamente recentralizadora por parte del gobierno español

es decir que además de reclamar su cumplimiento íntegro el estatuto actual respeto y todo ello sin contar con la nueva amenaza que supone ciudadanos y su estrategia electoral al respecto en primer lugar hemos de felicitarnos por la iniciativa

del estatuto también por su actualidad y por el grupo proponente lo cual entendemos que tiene una gran significación política ongi etorria

y hemos llegado a una enmienda transaccional el grupo proponente socialistas nacionalistas y elkarrekin podemos a los que quiero agradecer su predisposición a llegar a este acuerdo

importante la denominación de este departamento señor erkoreka en su comparecencia para la presentación de las líneas generales de la actuación que era preciso poner pie en pared y reaccionar

está provocando en nuestro autogobierno todos los grupos firmantes hoy a la vista de lo manifestado por sus portavoces

por la gravedad de los ataques injustificados que está sufriendo nuestro autogobierno en los últimos años y por ello entendemos que en primer lugar es necesario reivindicarlo y defenderlo con firmeza de ahí el primer párrafo de la propuesta transada donde destacamos la importancia como garantía de la protección del bienestar y del progreso de la ciudadanía a la que representa y esta actitud recentralizadora del gobierno español que afecta gravemente a nuestro autogobierno se materializa

en primer lugar y era por donde iba la propuesta inicial de bildu de euskal herria bildu mediante la interposición sistemática por parte del gobierno español de recursos y conflictos de competencia sobre todo ante el tribunal constitucional contra las decisiones adoptadas por las instituciones vascas konstituzio auzitegiaren aurrean aurkeztutako ainbat eta ainbat errekurtso

ematen dizkio estatuaren berriro zentralizatzeko bultzadari nos parece que la política de recursos sistemáticos del gobierno del pp

persigue limitar nuestro autogobierno aprovechando el pretexto de la crisis económica y esto hay que denunciarlo y hoy nuevamente lo denunciamos los últimos ejemplos de esta estrategia recentralizadora del gobierno español vía recursos los tenemos en la sentencia del tribunal supremo que anula

vulnerando nuestra capacidad de auto organización de la función pública competencia explícita de los apartados dos y cuatro del artículo diez del estatuto de gernika y también recientemente

de protección medioambiental para la extracción de hidrocarburos no convencionales y la fractura hidráulica creemos que se está potenciando la judicialización de la política de manera interesada el gobierno español ha tratado de obstaculizar vía recursos vía judicial las acciones legislativas del parlamento y las decisiones del gobierno vasco politikari

euskal erakundeek ordezkatzen dutenari muzin eginez hay una voluntad política más que jurídica de llevar adelante estos recursos desde el año dos mil once vivimos una estrategia política de bloqueo del gobierno español para con las instituciones vascas la presentación de recursos uno detrás de otro contra las leyes y las decisiones adoptadas en euskadi ha sido la dinámica seguida por el gobierno popular creando una situación de bloqueo nosotros no queremos auto engañarnos y desconocer la realidad

y en política también pueden existir discrepancias diferencias y conflictos

y que estos pueden acabar o resolverse ante un tribunal que imparta justicia por lo tanto el problema no es la existencia misma de conflictos ni la existencia de tribunales que dirimen estos conflictos

radica en que estos conflictos no se gestionen o resuelvan con lealtad y objetividad y no se trata de un problema cuantitativo sino cualitativo en estos recursos y conflictos constitucionales a los que nos referimos el estado español y las instituciones vascas carecen de los mismos mecanismos procesales que garanticen

de manera que es el estado español quien se encuentra sistemáticamente en situación de privilegio por dos razones de índole política que suponen a nuestro juicio un abuso consideramos un abuso la utilización sistemática cuando se recurre por el estado del privilegio de suspensión automática

trataera berbera izan beharko lukete y segundo por otro lado

del tribunal constitucional mediante una composición que no respeta la pluralidad y es desequilibrada ideológica y territorialmente

descaradamente proclive a sostener las tesis del estado

en la ponencia autogobierno hace año y medio para poner de manifiesto estas afirmaciones

y mientras no se modifique el actual marco jurídico vigente con el propósito de intentar recuperar la idea de que la justicia es o debe ser independiente se debiera modificar

de sus miembros a fin de que sea más ecuánime a nivel político y que le permita presentarse como un auténtico árbitro imparcial en los conflictos entre poderes territoriales

bai ideologikoko bai lurraldetasunari dagokionez por lo tanto la cuestión

pueden ser admisibles dentro de unos márgenes en un sistema político con una distribución territorial de poder político lo inadecuado entendemos que es la configuración de poder jurisdiccional llamado actuar de árbitro y también las reglas procesales

en ambas cuestiones el sistema español se muestra desequilibrado y por ello la propuesta transada además de denunciar esta injerencia en las facultades que esta cámara tiene atribuidos legalmente instamos también al gobierno español a intentar agotar la vía del acuerdo mediante mecanismos pactados basados en la bilateralidad para dirimir la posibles diferencias que pudieran existir en materia competencial que lógicamente pueden existir y a que respete la decisiones que en ejercicio de las funciones que legalmente tiene atribuidos

por un básico principio democrático y al gobierno vasco se le insta a cumplir lo dispuesto en el programa de gobierno

y a continuar defendiendo las leyes y decisiones adoptadas en euskadi

y no utilizar a un tercero el tribunal constitucional para mejorar situaciones políticas y la segunda forma de ataque a nuestro auto gobierno

iniciativas legislativas estatales principalmente legislación básica y decretos que han afectado y afectan negativamente

al recortar reorientar y limitar las competencias y capacidades reconocidas

el uso abusivo de este tipo de legislación básica del estado es uno de los verdaderos problemas que han minado de facto el autogobierno en estos últimos años en materia de función pública en salud en educación en políticas activas de empleo en medio ambiente en derecho a la vivienda etcétera etcétera etcétera y queremos denunciar e instar al gobierno español

institucional y competencial de nuestro autogobierno y antes de finalizar una referencia que hacia el señor martínez

a la negociación a quienes pactan con el partido popular que no se ha preocupado pactar con el pp bueno la forma de negociación política

pero sí que tenemos algún ejemplo como el que permitió que el gobierno de madrid el partido popular esa es una forma de negociar nuestra forma de negociar es distinta le puedo asegurar que el criterio que rige siempre

de los intereses única y exclusivamente de la ciudadanía vasca y esta forma de actuar parece que elección tras elección es reconocida y abalada por la sociedad vasca

ante un escenario grave y preocupante para nuestro autogobierno el abuso de la legislación básica por parte del estado los recursos sistemáticos interpuestos contra

y doctrinas muy lesivas para nuestro marco competencial hacen necesario reivindicar y defender con firmeza nuestro autogobierno y evitar y en su caso denunciar las actuaciones del estado que supongan una intromisión un condicionamiento o un recorte de las normas jurídicas y de las políticas públicas que el parlamento o el gobierno vasco hayan aprobado
en el ejercicio de sus competencias besterik ez eskerrik asko eskerrik asko zorrilla jauna

muchas gracias señora presidenta señor lehendakari señor consejero señorías buenas tardes a todos

y reconocer pues así lo han reconocido todos los grupos que estamos o vivimos todos los vascos como el resto de los españoles

darnos un ordenamiento jurídico darnos

que nos permite mantener que se fundamente y que nos permite mantener y desarrollar unas instituciones que son las que rigen la vida de todos los ciudadanos un entramado un ordenamiento jurídico francamente complejo y especialmente en euskadi porque nuestra actividad administrativa y nuestras instituciones son especialmente complejas

en el reparto competencial no tanto como en otras zonas de españa

este estado democrático está lleno de garantías tantas garantías que ha permitido a todos los portavoces

si no fuera un estado democrático si no fuera un estado lleno de garantías no

cómo funciona el tribunal constitucional a decir que sus miembros son parciales y que sus decisiones son lesivas como se ha oído

nosotros vivimos en democracia bienvenidos al club

y el reparto competencial es muy difícil y precisamente para evitar que unas instituciones que unas administraciones bien sean legislativos

los legislativos autonómicos nuestras juntas generales o nuestros ayuntamientos

de sus potestades o bien sean los ejecutivos el gobierno de españa los diferentes gobiernos autonómicos o los diferentes gobiernos forales puedan interferir unos en las competencias

dirimir las diferencias que existen si cogemos las iniciativas que hoy nos han presentado ustedes y le damos la vuelta donde pone gobierno de españa ponemos gobierno vasco

sus argumentos serían absolutamente los mismos pero

nuestro sistema nuestro ordenamiento jurídico y el sistema que tenemos para dirimir los conflictos ustedes han venido aquí a criticar al gobierno del partido popular que es el gobierno de españa en estos momentos claro ejemplo cuando el gobierno de españa decide tomar una medida que afecta

de los trabajadores públicos vascos está interfiriendo en nuestros derechos legítimos y en nuestro autogobierno perdón

entonces sí se interfiere y se erosiona nuestro autogobierno en cambio si el partido socialista y el partido nacionalista vasco lo que deciden es

no se erosionan nuestras competencias no se interfiere en nuestro autogobierno nunca

con el que se mire un hecho similar parecido que en derecho

que nunca dos hechos son exactamente iguales aquí hemos venido todos menos nosotros a criticar al gobierno del partido popular que realmente es el auténtico garante del autogobierno vasco y me voy a explicar

realmente lo objetivo lo que nos da singularidad frente a otros territorios es el concierto económico y es el cupo

el concierto económico y el cupo vasco en el año ochenta y uno por un gobierno de ucd creo que ninguno de los miembros de ucd eran ni de bildu ni de podemos

no del partido nacionalista vasco la mayoría pasaron al grupo

cuándo se hizo indefinida esa regulación del concierto con un gobierno del partido popular cuándo por fin se ha desbloqueado la situación que es la que nos da base a nuestras verdaderas singularidades y peculiaridades cuando el gobierno vasco y el gobierno de madrid se han sentado

y sin el gobierno del partido popular y usted señor lehendakari lo sabe perfectamente

renovar esas condiciones del concierto económico y de nuestro cupo es gracias

del autogobierno vasco porque los ataques a nuestro autogobierno no vienen de fuera

cuando aquí se toman en esta cámara se toman decisiones que pueden estar fuera del marco de la legalidad

una ley de vivienda en unos términos absolutamente similares a la que se ha aprobado en el parlamento andaluz y que el tribunal constitucional ha dicho

y nosotros decidimos aprobarla lógicamente sabemos que va a llegar el tribunal constitucional y nos va a volver exactamente a decir que estamos actuando fuera de la ley

en una comunidad autónoma parece que está bien si lo hacen en otra según ustedes pues no debe

a pesar de que ninguno de los portavoces de los grupos que han intervenido y han firmado el acuerdo nos haya llamado

no vamos a aprobar el acuerdo que tienen ustedes por qué lo saben ustedes perfectamente porque nosotros sí somos coherentes y nosotros sí mantenemos una posición política y jurídica muy clara en todos estos asuntos es por eso por lo que no vamos a apoyar la iniciativa que

han querido sacar adelante especialmente por el quinto punto que igual es el que menos importancia puede tener pero es que me parece un dislate jurídico

cuatro los nombra el congreso de los diputados cuatro los nombra el senado

dos los propone el gobierno de españa y otros dos el consejo general del poder judicial

que propone el gobierno porque aquí se insta al gobierno a que articule los mecanismos suficientes para que esos dos miembros no los otros diez sean plurales y tengan representación territorial creo que todos los grupos que estamos aquí presentes tenemos representación tanto en el congreso de los diputados como en el senado y ustedes nos están diciendo que no hay pluralidad suficiente en el congreso de los diputados señor erkoreka que me mira y sonríe sabe perfectamente que allí existe la pluralidad y más en estos momentos en que no hay mayorías absolutas

política el senado es una cámara territorial es la cámara de representación territorial por lo tanto entiendo que los nombramientos que hace sí respetan la

exigir al gobierno de españa que cambie el sistema de nombramiento que tiene de sus puestos por nueve años
en el tribunal constitucional nosotros no vamos a apoyar ninguno de los puntos de esta moción muchas gracias eskerrik asko ruiz de arbulo jauna

señor pastor de su intervención la verdad es que he

toda la primera parte de su intervención nos ha explicado usted que este parlamento y estas instituciones lo que nos han posibilitado es decidir sobre la policía vasca

decidir decidir decidir decidir y digo bueno pues es que a ver si va a resultar ahora que el señor pastor está más de acuerdo con nosotros de lo que él cree

a que con estas reflexiones que ha hecho que precisamente es una parte de lo que yo he explicado también en mi intervención siga usted

llegar a decidir igual llegamos a un punto común y de acuerdo en el que decidimos sobre todo también sobre el modelo de relación con el estado no es tan difícil solo es un poquito de ejercicio en esos términos señor

no lo ha dicho pero le he visto súper contento

me alegro mucho porque esta iniciativa viene de donde viene y entonces he dicho no me va a decir lo que todos los que están ahí están pensando y me quieren decir eso de que les oigo mucho bienvenidos al club al club de los que apoyamos y eso que ya sé que es lo que estaban pensando la mayoría de ustedes pues mire

y entonces mire le voy a decir dos cosas sobre el club una que gana mucho

y dos que la entrada va a tener que ver con dos cosas que si usted piensa que

con que vamos a vigilar y vamos a hacer propuestas para avanzar

que tenga todas las competencias y que nos permita decidir sobre todo y una segunda cosa el lehendakari primero después de la aprobación del estatuto salvo que mi memoria me falle y esté equivocada fue carlos garaikoetxea que está ahora en bildu no yo se lo digo simplemente como dato señor

mire hay dos cosas hoy es la segunda vez que se quedan ustedes solos la segunda

a la mañana se han quedado solos en lo que tenía que ver con la ley de memoria histórica

en esta cuestión que tiene que ver con la defensa sí porque van a ser nueve y el resto

no sé yo me lo miraría un poco y mire

y cuando habla usted de críticas al gobierno del partido popular pues efectivamente es que criticamos al gobierno del partido popular en lo que nos parece que es criticable

en contra de nuestros derechos y eso es lo que estamos planteando y eso es legítimo criticar y decir lo que pensamos pero mire usted ha dicho en relación con una cuestión algo que también se dice en nuestra enmienda transaccional

nos está dando la razón ha dicho usted hablando del concierto económico y hablando del cupo que las cosas se han desbloqueado hablando eso es lo que décimos en la enmienda que hay que intentar desbloquear las cuestiones hablando no por la vía de recursos al tribunal constitucional fíjese usted también está más de acuerdo con nosotros con los que proponemos la enmienda que lo que se piensa

seguramente las cosas serían de otra manera y eso es lo que prácticamente todos y todas estamos proponiendo como método de resolución en lo que vayamos a hacer después

las resoluciones de los tribunales españoles son muchas y muy diferentes y muy distintas pero mire

que echaba por tierra una resolución del tribunal supremo y del tribunal constitucional español y que decía

se vulneran derechos fundamentales y se han vulnerado derechos fundamentales y había habido una resolución judicial que decía todo lo contrario pero eso también pasa y sigue pasando

con una sentencia condenatoria y voy a terminar diciendo una cosa que me parece que tengo que decir porque

y como la ironía a veces no se entiende muy bien pues la verdad quiero que se entienda que es una ironía

sobre todos los recursos y sobre todas las cuestionen que tenían que ver

en relación a lo que estábamos hablando hoy y el señor erkoreka

me explicó algo que yo en casi treinta años de ejercicio profesional no hubiera sido nunca capaz de entender que para eso tenía que ir al tribunal constitucional y meterme en la página web estoy

seguramente no hubiéramos podido hacer esta propuesta eskerrik asko eskerrik asko

señor zorrilla hablaba usted de nuestras formas de negociación y bueno

del partido socialista a la hora de hablar del camino que llegó a que había un gobierno del partido popular

mire ha dicho usted que uno de los grandes problemas

y además estoy de acuerdo estamos de acuerdo pues mire cuando después de las elecciones del veinte de diciembre para

iba ciudadanos en ese paquete iba ciudadanos y gracias a nosotros

ciudadanos no tiene en este momento el poder que algunos estaban dispuestos a darles en el gobierno del estado porque nosotros ya habíamos advertido y ya veníamos viendo

de modelo de estado que tiene ese partido que por desgracia cada día más lo muestra y además

pero bueno tampoco tengo mucha pretensión de confrontar mucho con usted hoy porque creo que en general y aquí aludo a los

y que además es necesario era necesario que quizás

y de defender desde esta cámara precisamente la capacidad de decidir sobre nuestros asuntos la capacidad

que nos confiere el auto gobierno y defender los derechos que tenemos como vascos y vascas estas cuestiones no solo eso sino que además y ya se ha mencionado aquí pues un acuerdo de este tipo nos permite poco a poco seguir avanzando en acercar posturas en acercar posiciones de cara a la actualización de nuestro autogobierno porque lo que hoy hemos conseguido es un acuerdo amplio algo que desde elkarrekin podemos

es un acuerdo amplio que hoy sirve para defender nuestro autogobierno pero un acuerdo amplio

las mejores herramientas y para desarrollar las mejores herramientas que tenemos para blindar nuestras competencias para blindar nuestros derechos sociales y para encontrar la mejor forma

lo que corresponde es poner en valor algo que en principio podía parecer muy difícil

en una postura conjunta de defensa del autogobierno a partidos muy distintos desde los que reclaman el independentismo hasta los que nos reclamamos de la legalidad constitucional y la gran novedad es que eh bildu se avenga a poner en valor el autogobierno vasco

durante décadas en este país esa es la gran novedad y a mí me parece que es una buena noticia que hay que recoger que ustedes ahora reconozcan

dicho barbaridades pues creo que es un elemento digno de mención y digno de valorar por parte

y la crítica a las actuaciones que el gobierno de españa hace usando el tribunal constitucional al que nosotros no calificamos como malo o bueno porque sea español

es un problema ideológico de quién tiene una determinada concepción de españa y quién tiene otra quién tiene una concepción abierta

que es la que compone el conjunto del estado español y quién no la tiene

esto no es una dinámica de ataque a los vascos por ser vascos y llevar txapela no no

abarca todo el conjunto del territorio español vascos catalanes gallegos valencianos y andaluces por lo tanto no es un tema territorial

es un tema ideológico vuelvo a repetírselo no territorial de tener una concepción del país de una determinada manera o tenerla de otra

es un mecanismo institucional que nosotros respetamos qué ocurre que se ha hecho una manipulación del mismo y se ha olvidado de que representa adecuadamente y eso lo recogemos en la enmienda de transacción

que tiene este país como usted bien ha dicho adela asúa propuesta por cierto por este grupo político y propuesto por el parlamento vasco y aprobado por el senado se ha cansado como usted bien dice de presentar voto particular tras voto particular porque no coincidía en la interpretación que hacía

española también ella como el resto de miembros del tribunal pero con otra concepción distinta por lo tanto no es un problema de identidades es un problema de ideología política

tiene que pesar en este asunto y ahora hemos alcanzado un acuerdo un territorio común de defensa del autogobierno

y con una vocación neocentralizadora de la forma de entender este país y la aplicación

pero eso no se lo décimos solo nosotros a los señores del partido popular desde una trinchera que en otros aspectos hemos compartido en muchas ocasiones pensamos que no están haciendo ustedes

y esa forma de usar las instituciones del país es una máquina de fabricar separatistas en este país y eso lo vemos en cataluña y lo podemos ver espero que no llegue a más en euskadi también porque las cosas hay que actuar y verlas con inteligencia

y con sentido político y de generosidad a la hora de interpretar las leyes y las leyes no tienen solo una visión la restrictiva las leyes tienen capacidad de ser interpretadas

esa interpretación generosa y para eso está la reforma constitucional y vuelvo a dirigirme en este caso al pnv y también a podemos

e introducir las reformas necesarias para hacer este país más equilibrado y más justo desde el punto de vista territorial ideológico nos quedaremos muy satisfechos con un discurso
que atiende a los sentimientos pero que tiene pocos efectos prácticos eskerrik asko pastor jauna euzko abertzaleak zorrilla jauna zurea da hitza

ya que usted ha dicho que partiendo de este marco jurídico quieren llegar a otro escenario y ese marco es el que a pesar de todos los ataques recentralizadores que estamos digamos denunciando hoy y de otro tipo de ataques ha llegado hasta nuestros días y en base al cual

nosotros llevamos cuarenta años en él y nos alegrará que se suba

y no lo tome como reproche usted lo tomaba como reproche a su actitud de hoy no

y otros planteamientos que están realizando últimamente ya que la defensa de autogobierno no es algo entendemos que no es algo que incumbe exclusivamente al gobierno de turno

un empeño en el que nos impliquemos activamente todos y todas también la izquierda abertzale

cuando me refiero a la izquierda abertzale me refiero a la izquierda abertzale no me refiero a eh bildu

y la segunda trampa que me hace es la referencia al lehendakari carlos garaikoetxea

ya sabe de qué partido era respecto a podemos bueno pues simplemente

pero ha dicho no sé lo que tiene ciudadanos gracias a ustedes eso no lo sé lo sabrán ustedes pero sí que sabemos y es hoy certeza de que

tan demoniaco llegase al gobierno no obstante no obstante como le he dicho me quedo en que nos congratulamos de que una fuerza nueva como ustedes

exprese ese posicionamiento a favor del autogobierno actualmente y esperemos que así se mantenga tanto aquí como en otras latitudes del estado respecto al señor ruiz de arbulo pues bueno difícil papeleta la verdad hombre nosotros no nos hemos puesto en contacto con usted porque

y además no tenía ninguna enmienda de totalidad con la que negociar habla de la imparcialidad del tribunal constitucional que aquí hemos criticado su parcialidad hombre pues si quiere también hacerse trampas al solitario se las hace pero es evidente que

es evidente que tiene una deriva regresiva y recentralizadora de su doctrina

lo dice la minoría disidente del propio tribunal en esos votos particulares que cada vez son más claros nítidos y frecuentes y debiera preocuparles y también respecto a la parcialidad o no

una afirmación creo que un miembro que llegó a ser presidente del tribunal constitucional era afiliado del partido popular creo que el señor pérez de los cobos si eso es imparcialidad pues que venga

decir que el gobierno popular es el auténtico garante del autogobierno vasco pues es para nota señor ruiz de arbulo desde mi punto de vista dígaselo

que quieran acceder a una vivienda dígaselo a sus votantes que quieran un medio ambiente sin fracking

pensionistas que se han visto afectados por el copago farmacéutico

no perdía la ocasión para exigir al gobierno vasco flexibilidad en las condiciones laborales para los miñones en qué flexibilidad de las treinta y cinco o de las treinta y siete horas y media

finalmente señor ruiz de arbulo aclararle que la rebaja del sueldo del cinco por ciento de los funcionarios

revise sus apuntes y si lo que realmente y es sincero lo que le molesta es el párrafo quinto de la enmienda transada

composición del tribunal constitucional le animamos a que pida el voto por puntos que gustosamente aceptamos y vote a favor del resto eskerrik asko eskerrik asko

pues mire si es para defender nuestros principios y nuestro ideario político pues no nos da ningún tipo de miedo lo triste y pesaroso sería que para aunarnos a una mayoría

al que hemos mantenido siempre y del que nos sentimos muy orgullosos

nos hablaba usted de vulneraciones de derechos fundamentales porque lo ha dicho

podemos hablar de todas las vulneraciones de derechos humanos

durante muchísimos años lo diga una sentencia o lo diga el sentir popular y el corazón de todos los que estamos presentes

en lugar de llamar al señor erkoreka me llama usted a mí que toca las puertas equivocadas y me pide los informes sobre conflictividad estado comunidades autónomas durante la décimo legislatura la noveno la octavo la séptimo

del ministerio de hacienda y administraciones públicas que yo sí que inmediatamente se lo daré y no le remitiré a la web del tribunal constitucional

votantes jubilados tenemos que hablar con nuestros votantes trabajadores de la función pública tenemos que hablar con nuestros votantes jóvenes que quieren adquirir una vivienda yo le voy a recomendar a usted algo mucho más sencillo y es que coja usted el teléfono

con nosotros el partido popular y el gobierno está siendo exquisitamente respetuoso señor

no es una noticia vieja es un titular de esta mañana usted sube aquí a hablar de ataques al autogobierno erosión de nuestros derechos

que no comparte el mismo discurso no sé si porque no se entera o porque a usted no le ha explicado cuál es la verdadera posición de su partido en estos momentos eso para que usted no siga hablando de ataques recentralizadores y de partidos demoniacos de mi parte

y ya veremos dónde llega no voy a solicitar la votación por puntos yo le he dicho que el quinto punto es un dislate jurídico el resto los otros cuatro simplemente políticamente no los compartimos y como no los compartimos no los vamos a apoyar

para solicitar una votación por puntos como ya se ha hecho

para ir votando lo mismo punto por punto uno detrás de otro así que no solicitamos esa votación individualizada y desde el grupo popular nos vamos a oponer a la

voy a ser muy breve eskerrik asko isiltasuna

compañeras parlamentarias compañeros parlamentarios muy brevemente porque estar a las cinco y media

hambre de legislación y eso prestigia este parlamento su capacidad de control al gobierno por una parte y la confianza de la ciudadanía en nuestro parlamento

y marzo viene cargado es una moción muy sencilla la que tengo que plantear aquí muy brevemente porque

la interpelación hace unas semanas

la negociación de unas enfermeras en álava que llevaban muchos años en el programa salud escolar pues negociando con la dirección de la organización sanitaria territorial se les metió

en otras alternativas unas totalmente de acuerdo y otras de forma desajustada esa situación que tiene un perfil sindical más o menos nos permitió la oportunidad de plantear un asunto de calado que es la urgente necesidad que hablaremos a lo largo de la legislatura de orientar los sistemas de salud

como vamos no vamos bien la medicalización de la vida la tecnificación de los procesos diagnósticos y terapéuticos la organización de la oferta que hace osakidetza

no vamos bien es una situación compleja no solamente por el encarecimiento general de los procesos médicos sino porque no acabamos de tener tiempo para actividad comunitaria en los centros de salud no tenemos tiempo

salgan a la calle a los clubs de pensionistas a las escuelas

a los domicilios no tenemos tiempo porque la asistencia crea demandas a veces difíciles de manejar

es un sistema complejo de organización y como dice edgar morin pues los sistemas complejos hay que analizarlos con modelos de pensamiento complejo no me voy a meter en eso no me voy a meter por qué la gente va a consulta

por qué la gente consume medicamentos y antibióticos sin necesidad por qué las clases medias

más sencillas más populares por qué no me voy a meter en ese tema

voy a plantear la importancia la urgencia de que nuestros dirigentes reorganicen la orientación del sistema vasco de salud

como dice el plan de salud que está aprobado por toda la gente que estáis en este parlamento hasta el dos mil veinte

pues otros sí tienen objetivos claros de para qué valen los sistemas de salud

con la tecnología médica con el consumo de medicamentos y con una práctica clínica desbocada en el consumo yo

que estoy feliz de estar aquí a estas horas y que estoy contento porque los cinco grupos

esfuerzo en convencerme es una satisfacción en llegar a ideas generales de base

ya tendremos tiempos de polemizar en cuestiones concretas separación pública privada por qué la privada crece más que la pública ya tendremos tiempo de polemizar

debe ser mejor como osakidetza no debe dejar grupos desfavorecidos detrás

no puede permitirse tener huecos en la oferta que hace asistencial necesitamos reorientarla a políticas de salud como bien dice

y como bien se plantean en las estrategias de promoción de salud que son los contenidos

dirige a los gerentes de las osi a los gerentes de nuestros hospitales a los y las gerentes de nuestros centros de salud no es el plan de salud el que marca son los planes de empresa son los planes de demanda y demandas no son siempre necesidades a veces las demandas en nuestros centros de salud en nuestros hospitales en nuestro sistema de urgencias expresan necesidades no siempre la cultura del consumo sanitario tiene que ver

solo quiero leer muy brevemente a las ideas de tipo general

eva blanco gracias natalia rojo gracias laura garrido hemos llegado a las siguientes propuestas que son propuestas de sentido común que están en el plan de salud que están en el último documento que nos ha regalado el departamento de salud retos estratégicos de osakidetza dos mil veinte

en ninguna parte para que la promoción de salud el propio plan de salud y su divulgación las estructuras locales de epidemiologia y

no encontramos presupuestos no encontramos presupuestos

sin presupuesto ya lo hemos planteado en los momentos que tuvimos que plantear en los momentos de los presupuestos pero bueno tendremos tiempo de hablar despacio a que hemos llegado primero

entre otros desde una visión multidisciplinar e integral poniendo especial atención a la población infantil

los tiempos de nuestros profesionales la incentivación de nuestros profesionales los objetivos de trabajo en cada equipo sanitario tiene que responder al plan de salud

segundo las actividades de salud comunitaria especialmente en el ámbito local y crear nuevos canales de comunicación en coordinación con los ayuntamientos centros educativos y otras entidades vinculadas a iniciativa de salud comunitaria

el tener actividades en salud y hacer caminos saludables para los

treinta euros ha disminuido el diecisiete por ciento la subvención de salud pública en las redes locales que es el chocolate del oro hombre si vale mucho menos que cinco resonancias magnéticas nucleares y dos aceleradores lineales

reparta proporcionalmente los presupuestos de acuerdo con los objetivos estratégicos que usted mismo marca señor consejero

no hay dinero para las redes locales osasun sarea esaten da no hay tercero

alimentación saludable actividad física alcohol tabaco adicciones relaciones afectivo sexuales etcétera cuatro

hacia nuevas fórmulas de organización más modernas más eficaces y más eficientes que permitan adaptarse a las nuevas necesidades de salud evitar duplicidades

medicalización de la vida especialmente en la población infantil si no hay estrategias de promoción de salud si no hay una actitud proactiva de nuestros profesionales hacia la gente sana

en euskadi con nuestro nivel de riqueza es nuestro problema las necesidades de salud desiguales de la población

de prevención de cáncer de mama por qué el treinta y tres por ciento de las mujeres no están ahí pues porque los sectores más desfavorecidos tienen problemas de acceso cultural pues haz política proactivas dónde se muere más de cáncer en la margen izquierda pues haz políticas proactivas de detección en esos grupos vulnerables

por qué no va el treinta y cuatro por ciento al plan de atención dental infantil quiénes son pues los sectores más desfavorecidos los que están en el borde de la exclusión social pues haz política proactivas con esos grupos que tú sabes quienes son porque tenemos buenos sistemas epidemiológicos sabemos quiénes son

proactivas a la población sana o en riesgo que sabes que tiene desigualdades en salud tiene desigualdades qué son desigualdades en salud que la gente se enferma muere

y acabo ya cinco fomento de la cultura de la evaluación orientando a las organizaciones sanitarias integradas hacia la mejora continua en la gestión y en los resultados asistenciales y por último un asunto que está

me ha alegrado mucho definición y desarrollo del modelo de atención para la enfermería el rol de nuestras profesionales de enfermería hay que redefinirlo incentivarlo y orientarlo en los centros de salud hacia la calle el setenta y dos por ciento de las mujeres en euskadi mayores de sesenta y cinco años viven solas del documento de

setenta y dos por ciento de las mujeres mayores de sesenta y cinco años viven solas

sabemos tenemos todos los datos tenemos buenos sistemas de información la enfermería los fisioterapeutas los médicos de familia tienen que estar en el domicilio

no hay tiempo no hay plantilla plantilla es que estamos un poco pues eso hay que negociar

hacia la salud de la gente definición y desarrollo del modelo de atención para la enfermería en osakidetza

afrontar las necesidades de salud de nuestra población actuales y futuras y la nueva realidad profesional eskerrik asko eskerrik asko uria jauna

bueno yo creo que satisfacción porque en el acuerdo alcanzado hemos logrado centrar el debate señor uria me reconocerá usted que de la interpelación y la moción sustanciada posteriormente a raíz de la interpelación sobre las actividades comunitarias de la osi de vitoria gasteiz era un tanto confusa usted nos ha hecho además algunos

la situación del personal de enfermería propiamente como tan pronto también nos hacia un discurso un tanto nostálgico

de salud escolar instaurado en los años ochenta a principios de los años ochenta y como usted sabe todo el tema de salud escolar ha sufrido una evolución

a la prevención promoción de la salud con los equipos actualmente existentes en atención primaria

yo creo que señor uria nos tiene que estar muy agradecidas a la señora rojo larrauri blanco

hemos conseguido centrar el debate en el acuerdo finalmente alcanzado y como guía tengo que decir que este grupo a la hora de

planteamientos contemplados en el plan de salud creo que es un documento importante como guía de actuación en el sentido en que se marcan las líneas de estratégicas de la política sanitaria en un periodo lo suficientemente amplio y hay que decir que todavía

hemos tratado de introducir algunas cuestiones importantes por lo tanto satisfacción creemos que hemos centrado el debate y nos hemos además hecho referencia a las cuestiones que realmente tenían

específica en relación a la prevención y la promoción de la salud por eso nosotros hablábamos de promoción de hábitos de vida saludables prevención de conductas de riesgo

y teniendo como foco de atención especialmente a la población infantil

también hacíamos referencia en nuestra enmienda que ha sido recogido en el acuerdo las actividades de salud comunitaria especialmente en el ámbito local

y otras entidades vinculadas a las iniciativas de salud comunitaria actuaciones específicas sobre los determinantes de salud en el ámbito

había mucho que hacer por parte del departamento de salud u del gobierno vasco era la inclusión en el currículum escolar de contenidos relativos a conductas saludables todo lo que tiene que ver con alimentación saludable actividad física alcohol tabaco adicciones y relaciones también afectivo sexuales

evitando duplicidades creo que es algo también que queda claro en el acuerdo alcanzado finalmente una previsión que también consideramos interesante que también viene en el plan

el fomentar la cultura de la evaluación de las políticas que se ponen en marcha y orientar las organizaciones sanitarias integradas hacia la mejora continua de la gestión y los resultados existenciales

para la enfermería también con el objetivo de

en salud que tenemos también con una población dependiente importante y

envejecimiento de la población se producen por lo tanto pues esto es lo que hay señor uria yo creo que puede estar usted contento y sobre todo porque pues nosotras las parlamentarias que he nombrado finalmente hemos centrado un debate yo espero

y las cuestiones específicas que se mencionan el gobierno también

promueva iniciativas concretas en relaciones a los ámbitos concretos a los que nos hemos referido nada más muchas gracias eskerrik asko garrido andrea

beharko zen orain egiten ez den lana egiteko y dentro de toda esa reorganización de

programas que ya están en marcha y que deberíamos de impulsar como el programa mugimen que es un programa del gobierno por eso lo incluíamos en nuestra

y en este caso y compartiendo que las diferentes zonas y osi llevan ritmos diferentes

también consideramos que hay líneas de actuación comunes a todas las organizaciones

y para nosotras es interesante y conveniente impulsar hábitos de vida saludable entre chicos y chicas educación para la salud que se dice profundizando en la promoción de la actividad física formando en cuestiones como la educación sexual información sobre el consumo de drogas cómo hacer frente al estrés como hacer frente al acoso escolar por ejemplo

habla en clave comunitaria y sé a lo que se refiere el señor uria pero cuando se habla de programas

de los centros de salud cuando se habla de grupos de población específicos de población inmigrante de mujeres o asociaciones de personas mayores de rehabilitación domiciliaria de atención a pacientes crónicos o terminales suponemos que se quiere ir más allá de repartir aspirinas de tomar la tensión o de hacer curas

pretende es prestar una atención integral a todas las personas en diferentes ámbitos

a los colectivos más vulnerables por las causas que sean

y los cuidados que necesitan por eso precisamente en nuestro segundo punto hablábamos de la necesidad de impulsar el modelo socio sanitario asegurando los recursos

que sean necesarios durante este proceso parecía que éramos el único grupo parlamentario que opinaba

pero el señor uria en su primera intervención lo cierto es que lo ha nombrado eta egia esan badakigu uria jaunarekin adostasun arazo bat izan dugula puntu honetan

reconozco que no ha sido fácil amalgamar los diferentes conceptos que aparecían

de manera que se entienda para plasmarlo en una enmienda a la totalidad

por nuestro lado se hablaban de resoluciones de plan de salud otros hablábamos de otra cosa bueno

gracias presidenta y buenas tardes a todos bueno efectivamente el señor uria nos trajo al pleno

darpón una interpelación que era un poco que el título parecía bastante concreto cuando uno lee la intervención que el señor uria hacía hablaba luego de muchas cosas y se ampliaba mucho más el objeto que ese título inicial planteaba efectivamente hoy nos dice el señor uria que esto parte de una situación concreta de un grupo de enfermeras concretas en un lugar concreto y que a partir de ahí

plasmar la preocupación que tiene en este caso elkarrekin podemos con la necesidad de reorganizar de intentar apuntar un poco mejor en la organización que se tiene

cuando el señor darpón le contesta esa parte más concreta y llega la moción

es complicado para los grupos que no somos los proponentes presentar una enmienda transaccional porque se hablaba de muchas cosas y nos resultaba un poco difícil atinar

que cada uno como decía la señora blanco hemos apuntado a cosas bastante variopintas pero que usted señor uria de una forma muy generosa ha aceptado recoger todas

tenga tantos puntos y se hablen de tantas cosas que yo me alegro mucho porque creo que es la primera vez que en un tema de salud hay unanimidad por tanto señor uria creo que debemos de felicitarle a usted que es bastante insistente con estas cosas que a veces parece que solo entiende usted pero en la que nos vemos todos implicados entonces

la organización de la que usted habla viene de hace cuarenta años y que efectivamente se ha tenido que ver sometida a unos cambios no siempre gustan a todo el mundo como parece que no gustan a ese colectivo de personas a las que se refería pero que efectivamente

vayan saliendo bien por eso entiendo que usted comparte con el gobierno y con todos los grupos que las cosas aunque se pueden mejorar efectivamente se van haciendo

no existían la mayoría de los centros que tenemos hoy no había los programas y los planes que hoy ha podido desarrollar osakidetza

que podemos hablar de hábitos saludables uniéndolo al ámbito de la educación a políticas de prevención de enfermedades a la necesidad de coordinación de unos departamentos y de otros y así podríamos hacer casi una enmienda transaccional que fuera más larga que ese

por tanto yo creo que hoy por intentar centrarnos el tema era la osi de vitoria gasteiz y lo que hemos recogido creo que abarca incluso mucho más que eso creo que

presente y ojalá esté en las manos de todos seguir trabajando con una unanimidad como la que vamos a votar en breves minutos y seguiremos ahondando en el tema pero sí que es verdad que convendría que casi las

enmiendas aunque no es obligación hacerlas podamos atinar y así lo que aprobemos vaya efectivamente relacionado con lo que hemos venido a hablar nada más muchas gracias

finalmente hemos conseguido llegar a un acuerdo un acuerdo unánime sobre aspectos generales recogidos en otros planes o documentos en materia sanitaria y bueno el acuerdo siempre es positivo nosotros también nos felicitamos por el acuerdo y también

en este asunto pero tal y como ha manifestado usted conclusión a la que por cierto ya habíamos llegado

como consecuencia de una reubicación venida como consecuencia de un cambio en un programa de salud concreto el programa de salud escolar programa que como hoy ya se ha dicho es un programa de los años ochenta

atención primaria y previo a muchas de las referencias sanitarias que hoy en día conocemos y este programa es verdad que ha sufrido un cambio pero no hay que poner en duda que por un lado se han garantizado en todo momento los derechos laborales

y las necesidades que existían en aquellos momentos en la organización en la medida de lo posible siempre en la medida de lo posible acordando y desde luego aprovechando su larga experiencia

adoptado a las necesidades actuales sin merma en la calidad de los servicios y manteniendo la sostenibilidad del sistema y usted señor uria

aprovecha para poner en cuestión todo el modelo y no no lo estimamos del todo correcto y además ese cuestionamiento del modelo entendemos que debería enmarcarse en otro debate y no en un debate

contenido inicial y además probablemente nos daría para varios plenos monográficos

apostamos por seguir impulsando y promoviendo la prevención y promoción de la salud

no es competencia la prevención y promoción no es competencia de nadie en exclusiva también

por lo tanto el perfil comunitario sigue garantizado y también apostamos por seguir avanzando en nuevas fórmulas de organización más modernas eficaces y eficientes

por lo tanto defendemos un modelo de atención sanitaria integrada en la que la salud escolar es parte de la atención primaria ya es parte de ello por lo tanto defendemos un modelo que

el recogido en el plan de salud vigente y no hay que poner en duda que

y está trabajando por reforzar especialmente la atención primaria

insistimos en que no se puede poner en cuestión que por unos cambios hay una merma en los servicios en la calidad

las situaciones laborales de las personas y como se ha dicho pues la osi araba hace unos meses decidió además en coordinación con el departamento de educación decidió redefinir el contenido y funciones del servicio de salud escolar

tenía un contenido concreto relativo a la asistencia sanitaria a los escolares pero que con el posterior desarrollo de otros programas de salud como el programa de salud infantil y de los equipos de atención primaria pues ese contenido se ha ido absorbiendo

por lo tanto y en cuanto a los profesionales en este proceso de adaptación que ha sido un proceso que ha durado un tiempo se ha tenido en todo momento

tenía ocho personas ha acabado con cuatro personas porque se ha entendido que era adecuado en todo momento

el tema ha sido consensuado y el equipo se ha encuadrado además en atención primaria

por lo tanto no ha habido ningún menoscabo y usted habla también de la solución que se ha dado en otras osi que ha sido diferente efectivamente

porque cada osi es diferente porque la solución de integración se ha producido en un momento diferente porque los puntos de partida de cada organización son diferentes

son los mismos por lo tanto se han dado unas soluciones probablemente parecidas no iguales porque no pueden ser iguales pero no hay una referencia única ninguna

la solución que le conviene que le es más adecuada a él y en cualquier caso en la mayoría de las osi a día de hoy no se cuenta con un equipo específico

y bueno y por todo ello y haciendo una agrupación de todas las peticiones de los grupos y entendiendo además que venían de documentos que

hemos llegado a un acuerdo en el que se impulsa y se sigue y se pide seguir profundizando en aspectos en unos aspectos generales

a la población escolar con un cambio de organización que evita que pudieran producirse duplicidades innecesarias e ineficiencias en el sistema

y sí el gobierno sí tiene políticas proactivas en materia de salud señor uria eskerrik asko

lehendakari compañeros y compañeras perdonar este exceso de tiempo

insistir en el agradecimiento a los grupos políticos porque se ha logrado un consenso diverso

estoy convencido de que este parlamento tarde o temprano va a votar un pacto en defensa de la sanidad pública vasca

proposiciones no de ley u otro tipo de mociones que iremos presentando

estoy convencido de que es posible un pacto de defensa y necesario de la sanidad pública vasca político segundo

efectivamente hemos sido hábiles para mezclar los problemas concretos con los problemas generales de lo particular a lo general claro sí no hubiese problemas concretos que no lo hubiesemos detectado pues efectivamente no haríamos reflexiones más amplias sobre el funcionamiento de los sistemas por ejemplo de este parlamento

o de educación son los problemas concretos los que nos hacen reflexionar sobre la organización de los sistemas es lo que he hecho me habéis entendido perfectamente y por eso reitero mi agradecimiento

he hecho un poco de énfasis en la importancia de las redes locales de salud y extender la experiencia que en euskadi tenemos no somos tan grandes

si tenemos más de doce municipios con redes locales de salud

sabemos que es la garantía de que las estrategias de promoción de salud

una atención primaria con orientación comunitaria con orientación de promoción da mejores resultados en salud es más eficiente es más sostenible es más accesible y es más equitativo y efectivamente

la interpelación y la moción iban un poco en consonancia las enmiendas de los grupos parlamentarios hablaban de cosas diferentes

las intervenciones de las portavoces y el portavoz creo que pocas cosas tiene en común

de una cosa muy amplia y muy aceptable bien entre otras cosas porque aparecen propuestas de resolución del plan de salud que nosotras también en su día

decir que va a ser la última vez que por lo menos esta parlamentaria firme una enmienda transaccional que poco tenga que ver con la iniciativa original o con las enmiendas que metamos los grupos a eso nos vamos a ceñir exclusivamente y buenos pues felicitarlos por un acuerdo porque al final es un acuerdo

eserlekutik legebiltzar buru anderea nada sin más compartir el acuerdo

por el acuerdo y que compartimos plenamente con el señor uria los objetivos

ha manifestado el departamento de salud del gobierno vasco